de toda la vida a los responsables del régimen franquista y no depurar las estructuras criminales del ejército la policía y la judicatura era bueno para la recién nacida democracia sí también quisieron creer que era bueno para la democracia que el jefe de estado fuera el rey puesto por franco e incluso creyeron que salvó a la democracia el autogolpe

era bueno para esa joven democracia española porque la protegía de su propio ejército también hicieron

era imprescindible para modernizar la economía española es españa un caso único en toda europa donde tenemos

y al psoe como el otro gran partido de estado ese partido que se ha dedicado año tras año

siempre por el supuesto bien de esa joven democracia a neutralizar a todos los sectores críticos con la reforma del régimen franquista siempre en perjuicio objetivo de la clase trabajadora española el ruido de sables los engaños de unos pocos y la buena voluntad

han hecho que esta gran mentira llamada transición española haya durado treinta y siete años

se acabó esto no da más de sí la operación de estado que han puesto en marcha no va a detener nada ni el proceso exprés de cambio de rey ni el blindaje

o de latrocinio continuado ni un adelanto electoral ni una reforma constitucional

nada puede detener que cataluña y euskal herria se desaten porque la ingenuidad democrática de hace treinta y siete años

ni al catalán le valen cambios cosméticos para no cambiar nada no queremos la reforma de la reforma del régimen franquista

que hace treinta y siete años pudo hacer de aquel proceso una verdadera transición a la democracia el reconocimiento de las naciones que están dentro del estado español

eso es lo único que hoy le exige eh bildu al gobierno español desde este parlamento pero ya sabemos también

sabemos que no se le puede pedir democracia a un régimen heredero del franquismo porque por eso él lo dejó todo y a todos atados

por eso hacemos un llamamiento hoy a nuestro pueblo a sus gentes a sus ciudadanos y ciudadanas y a sus representantes políticos algunos de ellos presentes hoy en esta cámara para que hagamos un esfuerzo entre demócratas vascos y vascas

acuerdos políticos que tengan por objetivo la integración del derecho a decidir en el ordenamiento jurídico propio poder dar instrumentos jurídicos a los representantes de la mayoría social vasca para que a su vez estos puedan dar la palabra y la decisión a quien le corresponde a la ciudadanía

ni siquiera había aquí una previsión de qué estatuto qué vía estatutaria se podía vislumbrar es evidente que no hubo una ruptura democrática

y que la transición hacia un sistema de libertades un sistema político democrático bueno estuvo

por resortes del franquismo que se resistían a desaparecer eso es así y en el año ochenta y uno también se ha citado también hay un golpe de estado

pero en lo político sí tenía un modelo de alcance

las sentencias del constitucional qué es lo que sucede cara al próximo escenario se dice

pues nosotros desde nuestra posición política y una posición democrática creemos que lo que la constitución debiera hacer

es reconocer lo que existe hay hechos nacionales no reconocidos

no reconocido constitucionalmente debidamente o sea reconocer lo que existe el que la ley intente también resolver los problemas

es una buena terapia política ayer mismo un ponente nada sospechoso de confesar con ideas nacionalistas

la legalidad y la legitimidad política y democrática y puso ejemplos de lo que es el derecho a decidir que no existe según su propia posición pero también hablaba

de habilitar sistemas de consulta consultas refrendarias para conocer desde una posición democrática

y la necesidad y la obligación constitucional de negociar que se deriva de algunas sentencias como la de canadá

una posible reforma yo creo que tenemos que caminar por lo menos conceptualmente a pensar que los sistemas políticos

cuanto más profundizan en la democracia cuanto más principios democráticos incorporan

yo creo que anclados en cierto nerviosismo que a mí me llama la atención porque veo que hay un nerviosismo galopante aquí

apuntando incluso este tipo de reformas hay gente que confunde lo de la solidez con rigidez

sólido en sus planteamientos pero desde el punto de vista democrático tendrá que profundizar

y no confundirlo con rigidez porque la rigidez al final te anquilosa

si hay voluntad democrática que quiera superar determinados corsés yo creo que esa función

es la auténtica llave para intentar resolver problemas de convivencia porque de lo que se trata si de lo que se trata por lo menos es la de consolidar nuevamente una unidad no deseada la unidad de españa será más unidad si parte desde la libre adhesión si la adhesión

con lo cual te supone a ti un estadio de subordinación eso no es unidad

al mismo tiempo en doble dirección la libre adhesión o

entonces yo no sé exactamente ustedes en qué van a concretar las reformas constitucionales el partido nacionalista vasco ya hizo su propuesta de reforma

aquí se ha vuelto a aprobar ese principio hoy estamos en una ponencia de autogobierno ponentzia horretan nik uste dut lana badagoela batzuk esaten dute

la atención debida a este debate pues este humilde parlamentario que estaba controlando

porque creía que el plazo terminaba a las nueve cero que era cuando acababa

una enmienda y después han aparecido más enmiendas con lo cual el partido nacionalista vasco

estaba esperando a ver qué posiciones políticas había pero enmiendas

déjeme explicar la vuestra la del partido socialista sí estaba yo estaba atento estaba atento a la jugada

el partido nacionalista vasco no ha presentado enmienda entiende que los trabajos a desarrollar en la ponencia de autogobierno

en su caso si hubiera alguna propuesta de reforma constitucional también la trataríamos y hoy tendremos un debate más o menos

no sé si edificante ojalá todo se sume pero

no va a salir nada desde mi punto de vista no si quiere ya una certificación de cuál es nuestro modelo el suyo

evidentemente las enmiendas del partido socialista y las del partido popular tampoco

sabe que esa posición la que mantiene en su enmienda está más que desarrollada y recogida en múltiples resoluciones de este parlamento y que también el momento y el debate se tiene que producir allí donde toca en el momento de las propuestas concretas

egibar jauna denbora amaitu zaizu y creo que eh bildu sabía antes

que esa era la posición del partido nacionalista vasco por lo tanto puede deducir cuál es nuestra posición

o decir o plantear el partido nacionalista vasco que la moción es de upyd y la moción usted efectivamente uno sí sí uno y cuatro en europa

su propuesta su enmienda no se dé tanta importancia que esto no es un pleno de control al señor egibar se debate sobre nuestra propuesta sobre el modelo de estado me parece interesante que haya habido algunos grupos que hayan presentado también la suya

en fin el pnv siempre espera no haber que hacen los demás y después sentencia yo voto aquellos esta vez

hemos traído este debate porque queremos traerlo porque nos interesa a nosotros porque es lo mejor no para ver que hace el partido nacionalista vasco no nos interesa ya lo que hace el partido nacionalista vasco lo importante es lo que hacemos nosotros en cada caso quiero decir lo que cada uno defiende y en relación no voy a tener tiempo porque efectivamente es poco tiempo yo la enmienda del grupo socialista

vista como está planteada pues me parece que apunta a cosas interesantes el problema es que

el partido socialista creo que creo que el partido socialista no sabe lo que quiere

incordiar demasiado al partido socialista pero creo que en concreto no sabe lo que es el modelo federal yo entiendo el modelo federal como algo sinónimo a la igualdad y ustedes en

semejante a la suya en la que introducíamos algún término como el de igualdad y ustedes no han querido firmar yo en todo caso les quiero decir que el federalismo choca

de excepciones fiscales sí el federalismo choca con determinados privilegios el federalismo choca con tratamientos diferenciados o pactos fiscales

territorial y ustedes tienen un lío considerable ustedes más bien defienden un estado confederal o un estado federal asimétrico desigualitario

ya digo federalismo en nuestra opinión es sinónimo de igualdad no se trata de defender el centralismo nosotros defendemos la descentralización política defendemos un estado federal simétrico semejante al alemán

una españa unida y diversa políticamente descentralizada y federal dentro de una europa federal

respecto a la señora quiroga creo que usted ha hecho digamos un discurso excesivamente a la defensiva y ha planteado una enmienda

cuál es la propuesta del partido popular en relación al modelo de estado

en contra del partido nacionalista vasco yo creo que tenemos que intentar corregir esa actitud que algunos han mantenido demasiado tiempo de estar siempre mirando de reojo qué es lo que hace

lo que hace el nacionalismo solo sino sobretodo de plantear una propuesta alternativa cada uno la suya propia y tratar de convencer a los ciudadanos para ganar su apoyo yo creo que esto es lo importante se lo digo con todo

nuestro objetivo no era explicar lo nefasto que es el nacionalismo ya digo sino explicar nuestra propuesta plantear

de modelo de estado plantear nuestra propuesta de reforma constitucional creo que es un craso error en fin hacer bascular siempre nuestros discursos nos consideramos constitucionalistas en torno a lo que hace o no hace el partido nacionalista vasco creo que esto deberíamos corregir en fin en medio minuto es bastante complicado convencer

que lo mejor es que dejen de ser nacionalistas pero puesto que no tengo tiempo ni paciencia suficiente para intentarlo porque además es básicamente imposible yo únicamente les quiero decir que el modelo territorial del estado todos los españoles que la constitución española puede cambiarse y nosotros queremos cambiarla pero debe hacerse a través de los procedimientos legales establecidos y corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles y yo les quiero decir que esto es absolutamente

innegociable podrán defender sus propuestas pero el respeto a la legalidad vigente y el tener claro que el modelo territorial del estado y el futuro del país

y es absolutamente innegociable desde luego la solución no es más nacionalismo sino menos y más democracia es la solución y en ese sentido los nacionalismos pequeños han ocasionado

al conjunto de los ciudadanos españoles la solución no es más nacionalismo ni nacionalismos pequeños

son un grave problema para la construcción de europa y nosotros lo venimos defendiendo y venimos actuando en consonancia
con esos principios ni nacionalismos pequeños maneiro jauna amaitzen joan porque destruyen los estados actualmente vigentes

porque impiden la construcción europea en fin termino

el tiempo es escaso creo que era un debate necesario

y en todo caso la ponencia de autogobierno está bien que siga funcionando está bien que ahí

que traten de plantear sus ideas en todo caso nosotros estas propuestas que nosotros hemos defendido las seguiremos defendiendo también en la ponencia de autogobierno

sin temor ni temblor con el objetivo fundamental de que lo que hay que hacer es tratar de convencer a los ciudadanos

explicándoles nuestras propuestas consideren finalmente ellos eskerrik asko maneiro jauna

me va a permitir el señor maneiro que le dé encarecidamente las gracias por haberme dado
en un plazo de tiempo corto y además gratis un master de federalismo como el que nos ha dado en esta tribuna

igual que el otro por lo tanto lo que usted defiende es su modelo tan válido como cualquier otro

el nuestro es un modelo federal muy uniformador y como la realidad de españa no es precisamente uniforme sino diversa nosotros queremos que el modelo que planteamos recoja también

por los problemas sociales que tienen hoy los españoles y por los servicios públicos que ven amenazados y por eso no coincido con el señor arraiz que parece que el gran problema que tiene españa

la crisis de la constitución española y del sistema político la desconfianza de los ciudadanos hacia la política

es bastante más profundo y tiene más que ver con la concepción de la democracia que tienen los españoles y con la insatisfacción que tienen por un modelo político que ya no satisface esas expectativas

y habla del bipartidismo y habla de la gran mentira pero yo le voy a decir una cosa cuando se empezó a hablar de eso que usted llama transición democrática

quienes más apoyaron aquella transición democrática sabe usted quiénes fueron entre otros los miles de milicianos del partido socialista que habían peleado en la guerra civil por defender las libertades

que lo que se perdía en la transición democrática y por eso no puede usted hablar del partido socialista

porque si alguien se ha dejado la sangre en este país ha sido el partido socialista

del pnv que pelearon por defender la democracia y a los que usted no puede insultar diciéndoles que engañaron a la ciudadanía española no señor

disfruta y para gran mentira la de ustedes porque con ese mito de la ruptura democrática han estado entreteniéndonos

y no puede venir usted ahora a modo de sepulcro blanqueado dándonos lecciones de ética de democracia y de defensa de las libertades en este país porque su historia no se lo permite señor arraiz siento mucho decírselo y me alegro mucho de que estén hoy jugando

y por lo tanto en esa ruptura democrática es donde ustedes han instalado la gran mentira de querer justificar su actuación durante por desgracia décadas en este país y no es precisamente para estar orgullosos ni mucho menos y después el señor egibar al que le agradezco el tono critica también la transición democrática yo antes de oírlo hablar estaba apuntando que iba a decir usted transición democrática loapas conspiración

repetir a ser posible colocándose ustedes en el epicentro universal de todas las conspiraciones que están pensadas siempre para fastidiar al partido nacionalista vasco y piense de verdad

para esto porque todo aquello que dice usted loapas golpe de estado y toda esta historia afortunadamente fuimos capaces de superarlo

y de volver a reivindicar y mantener el estado de derecho y la defensa de las libertades y yo coincido

tener en la mano esa simbiosis entre la legalidad y la legitimidad y el reconocimiento de las realidades

habla de reconocimiento de su realidad o de su visión política de lo que es esa realidad y el reconocimiento de la realidad vasca

tan legítima como la suya y también se tiene que poder reconocer y en eso empezamos a tener una cierta diferencia porque reconocer una realidad no significa asumir el argumentario político de aquel que defiende ese criterio sino el de la pluralidad de la sociedad vasca

ponencia de autogobierno para reconocer y darle cauce a su visión

y a la de esa bancada de enfrente y si no somos capaces de hacerlo de esa manera
la ponencia de autogobierno no serviría para nada eskerrik asko pastor jauna

después de este debate de esta primera ronda señor

fíjese el partido popular venía a este debate y hemos defendido además la necesidad de que se celebrara este debate y que pudiéramos debatir cuantas veces haga falta en estos momentos

porque nos preocupa no tanto lo que plantee el partido nacionalista vasco salvo porque es el que tiene que liderar en estos momentos este país porque es al lehendakari del partido nacionalista vasco

y lo que nos preocupa es que no se buscan puntos de encuentro

y nadie trabajando por esos puntos de encuentro y nuestra enmienda parte de ese punto de encuentro del punto de encuentro de lo que son nuestras instituciones

refrendada sí en referéndum por la sociedad vasca y del estatuto refrendado también por la sociedad vasca esa es la realidad aquí hemos escuchado diferentes argumentos incluso hasta historias que dan miedo de lo desmemoriadas que son y que se intenten imponer en esta sociedad

una historia que no se corresponde para nada con la realidad y usted lo sabe usted lo sabe pero necesitan construir esa historia la necesitan

desde el franquismo hasta aquí para que nadie les recordemos donde han estado durante todo este tiempo

una y otra vez pero saben que no es verdad que ustedes renunciaron a estar en la democracia y se pusieron del otro lado

del lado del terrorismo del lado de los que quisieron dinamitar la democracia

en otro y lo saben por tanto lo que me preocupa en este momento es que no seamos capaces

usted nos dice que tenemos que tener una constitución o una nueva constitución que nos reconozca si ya nos reconoce es que reconoce los tres territorios históricos reconocidos y su capacidad soberana en la constitución ustedes saben que eso está reconocido ahí

y nuestra capacidad de autogobierno y el concierto económico y con eso nosotros no somos federalistas

sabemos que acabaría con los territorios históricos lo sabemos con los derechos históricos y la responsabilidad de un lehendakari es la de buscar esos puntos de unión y ustedes pretenden llevarnos a saltar esos puentes

que supone que quieren plantear con el derecho a decidir eso es lo que estamos reclamando desde el partido popular que sean claros

porque es su responsabilidad y yo señor egibar escuchándole aquí

me parece que es todo lo contrario usted ha hablado

de quien se cree dueño de este país y del destino de este país

que hay muchas personas que tienen otra visión que no están enredados en si son más o menos vascos si son más o menos españoles que quieren construir un futuro juntos

de incertidumbre provocada por la crisis económica

y creemos que hay una alternativa y esa es la alternativa en la que está trabajando el partido popular vasco porque creemos que hay que poner en valor lo que ahora tenemos

claro que sí y para eso fuimos nosotros a la ponencia no para que un día sí y otro también nos hablen del derecho a decidir y nos digan que ustedes están en una táctica partidista

sin tener en cuenta los intereses de una sociedad que se está jugando su futuro por eso a mí me parece que hay que venir con más respeto

de hablar de unas opciones que lo que están tratando es de romper

la convivencia en esta sociedad y hay una responsabilidad muy especial del lehendakari y por eso nos parece que encima haga bromas con que no les da tiempo a presentar una enmienda con algo tan serio me parece que en este momento señor creo que está fuera de lugar esto es un debate serio porque lo que se está planteando es una ruptura social y creo que la sociedad

y desde el lehendakari que tiene que liderar esta sociedad ese es el debate que nosotros creemos que está pendiente en este parlamento que esperamos
que a lo largo de los próximos meses se pueda producir gracias eskerrik asko quiroga andrea

a los milicianos socialistas que combatieron contra las tropas franquistas pero yo mis críticas mi profunda crítica lo más profunda que he podido no se lo hacía a ellos ni mucho menos

y que han vendido la idea del socialismo han vendido a la clase trabajadora española era para ellos era para ustedes esa crítica

baina hori da arrazoia las razones habla

está directamente relacionado con el bienestar de los ciudadanos de este país directamente relacionado

sujeto político no constitucionalmente reconocido el pueblo vasco pueblo vasco

porque marco tabar expresó categóricamente cuáles eran sus recelos

de autonomía y los esfuerzos que tuvieron que hacer y las renuncias a las que también se plegaron

no admitía dos cosas una que ha citado usted el reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales el que de los territorios forales en el estatuto se pasara a pueblo vasco

esa era una razón la segunda la disposición adicional él decía que el planteamiento del partido nacionalista vasco introduciendo la disposición adicional no cerraba la puerta

no le voy a decir el razonamiento del no de alianza popular estamos hablando de ucd

de ucd también ahora en el partido popular el señor marco tabar sí sí

dijo cuáles fueron sus razones sus resistencias sus reticencias

dijo por lo tanto para la actualización de la voluntad política de la ciudadanía vasca representada en este parlamento tenemos esa ponencia

y quién sabe también nos podemos dedicar a modificar la constitución o hacer propuestas no serán coincidentes seguramente y ahí está la otra cuestión

nos distingue y nos distancia con respecto al partido socialista cuando hablamos

se mide y se siente aquí la condición de vascos

estamos discutiendo dentro de un marco y un foro parlamentario qué recorrido pueden tener las decisiones

que puedan significar una modificación una alteración del modelo de convivencia en el estado en el que en la actualidad

una mayoría parlamentaria aquí no se si será de cuarenta y ocho sobre setenta y cinco igual son más igual están los setenta y cinco parlamentarios no algunos socialistas que no me ponga siempre

bajo el pretexto de las reglas de juego y la legalidad vigente de que usted tiene un montón de amigos conocidos socialistas que piensan igual que usted y que lo que este parlamento libre y democráticamente decida no va a tener pase porque no coincide con su pensamiento

o por el consenso eso es ejercer el derecho a veto y así no hay solución yo creo que esa es la gran distancia

quien quiera proponer bien sea reformas constitucionales incluso al calor de las comparecencias de la ponencia autogobierno

pero es de lo que se trata de articular parlamentaria y democráticamente qué modelo qué estatus qué reforma del estatuto

derecho a decidir directamente relacionado con el bienestar de los ciudadanos cuanta más capacidad más fondo de autogobierno tenga este pueblo y esta sociedad afrontaremos de mejor manera la solución de los problemas que tiene la sociedad

una identidad nacional diversa plural pero vasca también vasca

señora presidenta señorías en primer lugar desde el grupo popular quiero hacer alguna consideración respecto a la justificación que eh bildu hace en la presentación de la iniciativa dice que las administraciones públicas son las principales compradoras de alimentos esto señor lazarobaster es sencillamente falso los principales compradores de alimentos somos

las administraciones públicas en muy contadas ocasiones son las que licitan las adquisiciones de alimentos generalmente son las empresas que realizan los servicios a quien corresponde la adquisición de alimentos para consumo en dependencias públicas y segundo y más indignante

dice eh bildu en el segundo párrafo de la justificación ante la decadencia que sufre el sector primario esto es literalmente falso

esto desde quien dice o presume de conocer el sector primario la transformación que ha sufrido el sector primario en los últimos cincuenta años

por no decir toda menos algún sujeto

día a día para ofrecer productos de calidad y seguros con prácticas de manejo sostenibles

hacen que hoy el sector primario sea un sector estratégico

es la agricultura junto con el sector servicio los únicos sectores que ganan en participación

y en generación de empleo en el dos mil trece las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero crecieron un tres coma nueve por ciento en valor

millónes de euros en dos mil trece lo que representa un dieciséis coma dos por ciento del total en nacional esto

las políticas que eh bildu propone para el sector primario sí pueden llevar a la decadencia

seguros desde el partido popular y también lo sabe el noventa y nueve coma nueve por ciento de los productores del sector primario del país vasco

pero que son decadentes ellos en sí mismos no el sector primario señorías además existe una razón legal que impide lo que el señor lazarobaster proponía en su iniciativa que las administraciones

y por eso los principios de contratación pública a todos los niveles se encuentran actualmente presididos por el marco jurídico de las directivas de la unión europea la diecisiete y dieciocho barra dos mil cuatro del parlamento europeo que su

normativa el texto refundido de la ley de contratos del sector público por lo tanto establecer

de proximidad o locales es contravenir la ley y esto señores de eh bildu ustedes no se lo permiten verdad esta mañana el señor

nos decía que ellos quieren un estricto cumplimiento de la ley y usted en la enmienda de transacción que ha pactado también se adaptado

verdad parece que existen movimientos en la unión europea que puedan modificar parte

pero a día de hoy lo que tenemos no puede ser aplicados

desde el grupo popular pensamos en el consumidor en el consumo que hacen los ciudadanos y ofrecerles los productos de nuestra comunidad autónoma de manera atractiva

a la biodiversidad los hábitos de los consumidores han cambiado y también los de la distribución que han modificado sus estrategias que enfoca su oferta

intentando atraer y fidelizar a un cliente cada vez mucho más racional mucho más austero y que efectúa compras cada vez más frecuentes y de menor volumen

adaptarse a esta nueva realidad con iniciativas que les asegure capacidad productiva y organizativa el binomio distribución productor están obligados a entenderse

lo que se está usando hoy son los convenios que les asegura rentabilidad en las explotaciones y los productores como le decía deben adaptarse a esta nueva realidad deben concentrar la oferta y dotarse de

para la transformación para la comercialización eso es lo que necesita el productor no que vaya la administración a su casa a comprarle los cuatro puerros que produce no

en su exposición nos hablaba de producto hidropónico como algo

como el ecológico y tanta calidad puede tener el hidropónico como el ecológico y tan próximo es el hidropónico como el ecológico

no solo el ecológico tiene calidad y seguridad alimentaria la agricultura tradicional la clásica también tienen calidad y seguridad alimentaria en esta comunidad autónoma por lo tanto creo que esos términos

sector primario de nuestra comunidad autónoma eso sí que es decadente

decadente no asumir la realidad y mentir de esa manera

sensatas oiga sensato es un término subjetivo las administraciones públicas lo que tienen que hacer primero es cumplir la ley legal que está establecido eso es lo primero que deben de hacer

que dice usted lo próximo o lo local es lo bueno

explíqueme españa es el principal productor de agricultura ecológica pero da la casualidad

está en alemania consumidor que paga un precio que da rentabilidad a la explotación qué hacemos

entonces ese producto tiene que ir a alemania y hay transportarlo claro

en la era del libre comercio no sé si se ha enterado por lo tanto señor

que son tercermundistas que no están para nada de acuerdo con lo que demandan los consumidores con los sistemas de producción usted está en otro mundo o sea usted habla de

a un kilómetro oiga existe otro mundo otro tipo de agricultura

no sé si sabe el grupo popular va a apoyar la enmienda de transacción pero tengo que decir que gracias a dios la enmienda se ha modificado

de manera importante primero porque no tiene un plan es un estudio muy importante segundo porque su iniciativa no se ha adaptado al marco legal y la enmienda de transacción

arratsalde on guztioi no imaginaba la presión que supone llevar el último punto del último pleno de la temporada

no obstante a pesar de la presión vengo de buen rollo hoy

a través de una pnl que recordamos no lo logró

escondió la jeringa de inyectar soberanía y se ha hecho con un bote de pastillas grande y dosificadamente nos va colando a pildorazos

el método es sutil pero solo le funciona en la medida que intente convencer al paciente y parte con el un método y una dosis de ingesta

lo traído hoy al parlamento es interesante incluso podría pensarse que factible pero en el fondo carecía de suficiente profundización

ya le señalé en aquel debate que en euskadi la aplicación estricta de la soberanía

vivir alimentándonos de túnidos anchoas verdel conejo huevos y vino como dieta sana y completa calórica vale como variedad pues no la es mucho incluso el pollo se nos acabaría en enero y la ternera en marzo o abril y se nos habría acabado

aunque la cifra es bastante elevada hezkuntza eta osasun sistema publikoek horiek bakarrik

horien ikuskapena recordemos que el decreto de producción artesanal se vio forzado a adaptarse a las exigencias europeas de no romper la unidad de mercado y obligó a que la norma pudiera reconocer como artesanos y recuerda

porque esa es otra cuál sería el concepto de cercanía para un hospital o un centro escolar de gasteiz qué huertas o ganaderías son cercanas las de legutio

no encontrarán de verdad en mí a alguien que se oponga a la apuesta por el consumo de productos de proximidad todo lo contrario

a quien no puja por apuestas estéticas baldías no ejecutables por una serie de muros jurídicos y normativos ondo geratu gintezke kataluniako parlamentua bezala

dezaketen para empezar no se podrá contar con nosotros para trocear hasta la mínima expresión los lugares donde se consumen alimentos comprados con fondos públicos

por otro tampoco creemos factible que pongamos por ejemplo

de gasteiz se convierta en rehén de un oligopolio de productores de proximidad los únicos que haya seguramente para una organización que consume diariamente

por cierto les recomiendo a todos la atenta lectura

práctico para la compra y contratación pública verde editado por el propio gobierno vasco el año dos mil diez

se explica que en la ue las directivas comunitarias como ya ha dicho la señora lópez de ocariz definen los criterios para compra y contratación

se precisa expresamente en el manual que siguiendo directivas de la unión europea no se pueden pervertir los concursos públicos para favorecer los productos más próximos

pero no se puede definir servicio de catering con productos locales porque la definición de local es discriminatoria

pues eso se puede poner el objeto de un contrato la compra también de alimentos certificados de calidad pero no productos de kalitatea

por cierto leyendo detenidamente ese manual sí descubrirán

para abordar diferentes problemáticas ambientales como el tipo de envases material y modo de funcionamiento de cocinas gestión de residuos tipo de energía

del aspecto exclusivo de pensar en la comida que hay que comprar otro asunto que también me preocupa si nos encontramos con una empresa vasca

leche de ganaderos de aquí y una cooperativa de ganaderos de aquí que embotella fuera de aquí leche de ganaderos de aquí a quién le adjudicamos el concurso con criterios de proximidad a cuál de los dos

si la proximidad es importante los productos ecológicos también y los de calidad no digamos a nosotros nos gustaría incentivar en la compra pública todos los alimentos

para una sola cesta de la compra es la administración pública las múltiples cestas de la compra de todas y todos los vascos suman infinitamente

como por cierto viene trabajando el gobierno vasco para lograr que las diferentes grandes superficies se vayan apuntando como también lo están haciendo a las compras de productos de euskadi y de proximidad que hacer kamasutras jurídicos para lograr que parte de las compras públicas de alimento sean locales eztabaidatu beharreko kontu asko

o productos ecológicos o productos con etiquetas de calidad pero sin contravenir normas de contratación pública en el marco de la ue y sin dejar de intensificar esfuerzos en que esos consumos los puedan hacer en los hogares vascos en fin

la venta y el consumo de productos de aquí así como analizar las posibilidades reales que la normativa ofrece para contratación pública de ese tipo de productos alimentarios

y no por hacer un plan que no tiene sentido si no analizamos previamente sus propias posibilidades como tal plan y en cualquier caso

que apoye la transacción porque sabiendo que sé que la comparte pues veo que ha aplicado el proverbio africano de si quieres llegar rápido camino solo y si quieres llegar lejos
camina en grupo pues eso muchas gracias eskerrik asko

gracias presidenta decía el señor tellería que no sabía hasta que punto podía suponer una presión el ser portavoz del último punto no le cuento a usted ser la última de la primera ronda y ya de la segunda ya hablaremos

yo quería señalar porque creo que algunos parlamentarios y parlamentarias

a qué viene este juego estas disquisiciones que estamos tratando con este asunto

el diecisiete de febrero de este mismo año por parte de veterinarios sin fronteras que nos dieron a conocer un informe sobre la compra pública en sistemas alimentarios locales y los impactos sociales ambientales y económicos sobre el que se basaba la campaña llamada cortocircuito que tenía como fin principal la revitalización de los mercados alimentarios locales buscando la implicación de las instituciones y responsables locales a favor de una alimentación saludable

y que actúe sobre el medio ambiente y la biodiversidad y los socialistas

esos objetivos dicho informe consideraba imprescindible y urgente la puesta en marcha de una política pública que impulsara y favoreciera las iniciativas de compra pública de alimentos basados en una producción local y que para lograr ese objetivo nos decían era necesario asumir político vinculante por parte de las administraciones autonómicas y locales que explicitase la voluntad de incorporar alimentos de proximidad y de producción familiar en las compras públicas alimentarias en los sectores que les competen

iniciativas de incorporación de alimentos de proximidad en centros públicos como puedan ser comedores escolares o residencias de ancianos

tanto de carácter territorial como local desde hace años promoviendo experiencias novedosas en este ámbito como lo ha sido la experiencia ekolapiko en donostia san sebastián desde el año dos mil siete

suponen profundos cambios en muy diversas materias como la alimentación la agricultura el modelo agrícola que tenemos el medio ambiente y cómo no también cambios en el consumo

de ver el consumo por parte de los consumidores los socialistas

de los criterios de proximidad calidad y medio ambientales en esa compra pública de alimentos como así lo hemos expresado tanto en el congreso de los diputados como en el parlamento catalán

que no se trata solo de una mera declaración de voluntad política y que la apuesta en práctica de determinadas políticas no puede convertirse tan solo en una cuestión de voluntarismo

políticas estrategias y acciones complejas que sin duda no van a resultar pacíficas y por eso compartimos y apoyaremos la enmienda de transacción

porque estamos convencidos de la necesidad de efectuar un análisis de las diferentes posibilidades de incentivar las compras públicas de alimentos con criterios de proximidad calidad y medio ambientales

y de la regulación de la unión europea con el rigor y el detalle necesario para que podamos realmente con conocimiento de causa saber el posible alcance

con esta propuesta entendemos que se da un primer paso importante para el futuro que va a permitir adoptar un compromiso político de acción con pleno conocimiento de causa con plena seguridad jurídica de hasta dónde y cómo

dicho objetivo compartimos la importancia de mostrar un compromiso político para establecer un diagnóstico productivo y llevar un proceso paulatino de adaptación de la compra pública de alimentos a la realidad vasca bajo el principio

y con el acuerdo de hoy damos un primer paso en ese sentido hoy no existe en euskadi la posibilidad real de producción global de alimentos para satisfacer

porque en nuestro sector la realidad nos dice que nuestro sector primario produce entre el tres por ciento y el cinco por ciento de lo que consumimos los vascos por tanto

esa demanda de la que se hablaba aquí esa demanda que genera además la propia administración autonómica si tenemos en cuenta los centros escolares los centros

competencia de la administración vasca y por tanto se hace necesario

saber y conocer hasta dónde se puede llegar o qué objetivos reales se pueden alcanzar en qué plazos y con qué rentabilidad social y económica para los productores del sector primario pero también para la ciudadanía en general y el acuerdo

hoy en esta cámara está en absoluta consonancia con los objetivos de esa campaña cortocircuito que nos presentaron aquellos comparecientes en febrero de este mismo año que por lo tanto se trata de intentar con la mejor de las voluntades y con la mayor de las seguridades jurídicas revitalizar los mercados alimentarios locales

y de los responsables locales a favor de una alimentación saludable que refuerce el entorno agrario y el medio rural y que actúe sobre el medio ambiente y la biodiversidad

e ir hacia un proceso de compra pública de alimentos progresivo participado con experiencias piloto pero adaptado a la realidad de hoy a la realidad de euskadi se trata de apoyar e impulsar iniciativas pero no de excluir a nada
así que muchas gracias eskerrik asko zuri

me dice usted que mire a una bancada y a la otra porque yo le digo y se lo repito que hay productores decadentes no hay sector primario decadente en el país vasco

usted no representa al sector primario que hoy apoya a bildu

a muchísimos por no decir al cien por ciento de los productores del sector primario y se lo he dicho alguna vez y algunos de ellos van en sus listas o iban en sus listas a esta cámara que para nada

por lo tanto usted y se lo tengo que decir claramente porque lo veo día a día porque no representa

y eso se lo repito por lo tanto no hay sector primario decadente en el país vasco hoy

la presentación anterior que aquí quien consume principalmente y hace el consumo somos los consumidores

insistimos es en hacer promoción del producto local y cuando habla usted de la proximidad me quiere decir en los

cuál va a ser el menú que pone usted por proximidad quiero decir vino a la mañana al mediodía y a la noche y así

los trescientos sesenta y cinco días del año señor lazarobaster es que francamente da la risa da la risa claro que sí

jaunak dauka hitza por un lado en mi

punto del último pleno pueda terminar un par de minutos antes hablo desde el escaño congratulándome de nuevo de la uninamidad que creo vamos a alcanzar falta la posición de upyd pero

y por último no creo aportar de momento a este debate ya muchas más ideas y digo de momento porque estoy seguro que la soberanía alimentaria a lo largo de esta legislatura nos va a traer inmensos momentos a este